bárcenas montoro botella

yo había traído aquí una moción para hablar de la modificación de los decretos curriculares

para reivindicar a la lomce una ley para la mejora de la calidad en la enseñanza que es

mire habrá que desmontar algunas mentiras aquí no se hacen leyes sin consenso porque es que llega el pp a cambiar la ley no no las leyes educativas en españa son la lode del psoe la logse del psoe la lopeg del psoe la loce que era del pp no llegó a entrar en vigor

todas las leyes del psoe desde que comenzó la democracia y la lomce vamos a ver si da algunos resultados a ver si llega a

desde esa bancada desde aquella bancada los socialistas upyd todos lo hacen por motivos absolutamente contradictorios

recorrido la lomce entrará en vigor y tendrá recorrido en españa porque no hay un modelo alternativo a la lomce porque ustedes no sabrán ponerse de acuerdo en un modelo educativo

son incapaces de discutir más allá de las mentiras y la demagogia

favorece a los concertados pero quién nos lo dice desde el país vasco vamos a dar lecciones cuando el país vasco con un cincuenta por ciento de nuestra educación concertada

de escuela concertada de españa nosotros vamos a decir que en madrid van a favorecer a los concertados si es en euskadi con el apoyo que recibieron las ikastolas privadas la comunidad donde más se ha favorecido a los concertados pero a quién quieren engañar ustedes a quién quieren engañar hablando

y quiere corregir los errores claro que sí

o es que ustedes piensan que no hay nada que corregir en la educación de nuestro país es que creen que las familias vascas

no saben que tienen retos y que quieren una educación mejor para sus hijos claro que sí

y de eso se trata no se trata aquí de que solo tenga legitimidad para hablar de educación la izquierda o los nacionalistas no es que si la logse se aprobó con ciento ochenta y uno diputados de trescientos cincuenta

diputados de trescientos cincuenta no le resta legitimidad digo yo porque llevamos

tiene más escaños tiene más respaldo en el congreso de los diputados

es una ley marco que respeta las competencias y si no dígannos ustedes que la van a recurrir pero

ustedes lo que van a hacer es ir a recurrirla pero es que se ha sido muy escrupuloso en el respeto a las competencias

upyd se cargaría absolutamente a las autonomías

a upyd pero es que esta ley es muy respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas

a nuestro sistema educativo para no tener diecisiete sistemas educativos contradictorios nosotros hoy defendemos una educación al servicio de una ciudadanía crítica abierta que mire al futuro no que se mire el ombligo necesitamos que no cargue las tintas en lo identitario eso es lo que necesitamos necesitamos una educación que no esté supeditada a los más radicales de este país no una educación

una euskal herria que ellos quieren tergiversar porque euskal herria que es un término que utilizó siempre la derecha vasca española euskal herria que es un término que no le gustó nada a sabino arana y por eso sacó lo de euskadi porque consideraba que euskal herria era un término de la derecha claro de la derecha española en el país vasco esa euskal herria que siempre fue una palabra que defendió y utilizó la derecha tradicionalista y carlista en el país vasco

aquellos sus tatarabuelos los que están enterrados en todos esos pueblos donde bildu gobierna con mayoría absoluta todos los tatarabuelos sí y los míos también

todos esos pueblos donde hoy gobierna bildu con mayoría absoluta todos esos pueblos sus cementerios

que por supuesto que hablaban de euskal herria pero hablaban de la euskal herria española eran aquellos que llevaban la bandera de españa y que construían una euskadi defendiendo lo que somos

tengamos que romper con los demás participando durante siglos de un proyecto común que es españa

sus tatarabuelos justo en esos pueblos donde bildu gobierna por mayoría absoluta

se encontraban los vascos que dieron la cara por euskadi y por una españa que contribuyera al progreso de todos los vascos y de los derechos de todos los vascos esa es la escuela que queremos defender la que reconozca nuestra historia sin mentiras la que no se inventen la euskal herria como si nuestra comunidad

y no podemos permitir que vengan ahora ustedes a tergiversarla a manipularla y desde luego a convertir nuestra historia en un arma arrojadiza entre vascos para

es posible que no nos encontremos en la ley todas fuerzas políticas en la nueva ley lo que sí nos vamos a encontrar con toda claridad es en un asunto de artículo único que diga derogar la lomce en esa nos vamos a encontrar

es decir han llegado a que todas las fuerzas políticas se encuentren en el no a su lomce y por cierto la loe

ahí se abren los conciertos por cierto la logse fue aplaudida por todos menos por ustedes y así con la loe que incluso entró la fere

todas las leyes socialistas han recabado sendos apoyos y fuertes y sólidos apoyos pero ustedes no han estado ustedes han perdido esa oportunidad y efectivamente derogaremos la lomce

por lo tanto no sé si llegará a entrar en vigor y ni si tendremos

se quedará sin perfil pero mire señora berriozabal me ha dado mucha pena

y me ha dado una pena tremenda porque mientras ustedes están haciendo un discurso de estabilidad

etcétera etcétera usted dice que yo

de celos por los consensos primero no veo consensos para empezar

los agentes educativos representantes del profesorado

que el mayor consenso de esta comunidad usted sabe cuando se labró

compartíamos gobierno de coalición y en el que las fuerzas políticas fuimos capaces de sacar un acuerdo político un proyecto educativo el pacto

ese fue el gran pacto que da estabilidad y sabe usted lo que yo pude haber hecho señora berriozabal

el decreto de dos mil siete de mi antecesor señor campos pero no lo hice y habría sido mucho más rápido

y sabe por qué no lo hice sabe usted por qué no lo hice

hay que emocionarse con la educación porque ese es el futuro de una ciudad ese es el futuro de un pueblo esa es la educación

y qué modifiqué modifiqué aquellos puntos

impedían que cada una de las personas se sintieran en su propia casa en la escuela solamente esos puntos señora tres puntos obviamente quité algunos euskalherrias exagerados como decir vamos a analizar las enfermedades infecciosas de euskal herria

digo yo pero como no nos jugamos nuestra vasquidad en el número de euskalherrias señora

porque era el espacio territorial de la lengua y la cultura vascas y eso se puede trabajar desde la actual vigente por tanto lo que yo quiero lo que mi grupo quiere lo que el gobierno lópez quiso y lo que queremos y seguimos queriendo

la educación se siga desarrollando y nos parece analista decir ahora vamos a construir la educación vasca

por favor respeto a la historia y por lo tanto no me gusta que usted diga que las políticas del gobierno lópez no fueron consensuadas en materia educativa ahí tiene usted los resultados el trilingüísmo la eskola dos punto cero la formación profesional no me diga eso porque eso es rebatible con cualquier hemeroteca no me dé pena con lo que dice no me dé pena por favor por tanto un poco de respeto a lo anterior

no suele venir mal nunca pero dígame usted qué es esto si yo cojo heziberri y me dice tareas preparación de la propuesta equipo directivo visto bueno del contenido del plan para su debate

y así sucesivamente dígame esto

pero a los papeles que nos suelen pasar que suelen pasar las consultoras

permitirá una mayor cohesión servirá de referente para hacer una marco del modelo educativo pedagógico propio en negro propio

mire de verdad un poco de en un momento en el que nos estamos todos esforzando por hacer que los extranjeros se sientan en su propia casa con nosotros cómo vamos a permitir que los nuestros que nosotros

la escuela tiene que ser el ámbito de acogida más comprensivo para el alumno y la alumna de tal forma que realmente ese alumno no sienta que la ideología prevalente de una gobierno coyuntural es

para esto es la escuela y para lo otro para lo otro para las ideologías están todos los centros religiosos

pero una institución no puede de ninguna de las maneras imponer una

pero no la puede imponer sobre un sistema educativo

y justamente creo que está claro y creo que podríamos ponernos de acuerdo pero por favor ese es el consenso no hay otro

finalmente votaremos a favor de la moción planteada por el grupo popular porque lógicamente estamos de acuerdo a que instemos al gobierno vasco a respetar el marco jurídico existente y la legislación básica que es lo que básicamente plantea esta moción y poca cosa más y votaremos a favor de la moción también porque compartimos el discurso de oposición

adoctrinadores del nacionalismo vasco que ha expresado el señor oyarzabal por lo tanto votaremos a favor de la moción más allá de las diferencias en relación

ya se votó y nosotros votamos en contra en el congreso de los diputados y dimos por cierto contundentes argumentos para hacerlo

nosotros obligaremos al próximo gobierno de españa a modificar la ley actual una ley que efectivamente no tiene futuro esta ley

adoctrinamiento operación politica imposición de postulados imposición de ideario y se me habrán olvidado un montón

no deben de darse ese tipo de conductas en ningún sitio lo que pasa es que

aquí no se da esa circunstancia y no se va a dar por tanto no se preocupe usted tanto deje ya de manipular y de tratar de confundir usted miente cuando dice todo eso sobre heziberri dos mil veinte

del documento encuentra usted una justificación para todo lo que ha dicho hasta ahora y ha dicho hoy señor oyarzabal realmente yo no tenía intención de entrar en su juego pero aquí el único que pretende adoctrinar ideologizar

en este caso los suyos los del partido popular es el señor wert

y ese ministro ha conseguido algo que parecía imposible que era aunar a una oposición de lo más variopinta en el congreso de los diputados

ese es el que adoctrina no el partido nacionalista vasco ni el gobierno vasco en absoluto usted lo sabe perfectamente pero pretende arengar a sus masas sin motivo a las pocas que le sigue y discursos como el del señor wert o como el suyo eso sí que son una fabrica

a mí lo que me da pena señora celaá es ver a una persona que ha tenido responsabilidades en el ámbito educativo recientemente

y faltando al respeto de los agentes educativos que tanto dice respetar eso es lo que me da realmente pena oso deigarria iruditzen zait

pero le vuelvo a dar la bienvenida a esa manera de proceder porque no creo que usted sea la más indicada no hay más que echar un vistazo a determinados programas que usted puso

usted ha citado y del que está tan orgullosa lo puso en marcha sin evaluación previa sin fijar objetivos sin consultar con nadie zuk gauzak

hemendik bertatik esandako hitzak nuestro sistema educativo se ha forjado en el acuerdo en el pacto educativo por ello utilizaremos toda nuestra capacidad normativa

siempre y cuando contemos con el apoyo mayoritario de este parlamento y de la mayoría de la comunidad educativa

jaunak aspaldi gainera vamos a españolizar a los niños

hitza muchas gracias presidenta

en esta tribuna hay un argumento que se utiliza con mucha frecuencia cuando se quiere rechazar una iniciativa

que no es oportuna como oíamos esta mañana que se ha tratado otras veces que no es un tema nuevo

es un argumento recurrente nosotros hoy traemos aquí los socialistas un tema del que se ha hablado con anterioridad
y que alguien puede pensar que es reiterativo isiltasuna mesedez muchas gracias presidenta

por el acierto de la iniciativa quiero decir entonces que

lo traemos de nuevo aquí porque los socialistas pensamos que la cuestión del diálogo social tiene vigencia en todo tiempo y lugar

es uno de esos temas que siempre tendrá en la agenda política una razón de ser debatido estudiado analizado y planteado además veremos que a día de hoy después de todos los pronunciamientos que en esta cámara ha habido en favor de convocatoria de las mesas de diálogo social ha habido varios vemos que hoy este asunto está en vía muerta

y no sabemos exactamente qué posibilidades tiene de que esta iniciativa encuentre eco

además esta moción que trae causa de una interpelación ya dio lugar a una primera impresión a partir de las palabras del señor consejero de que no veía apropiado la convocatoria apartándose ya de los acuerdos adoptados de compromisos anteriores y analizando también la enmienda del grupo parlamentario nacionalista vemos que hay

aunque cabe también pensar que en el terreno de las conjeturas que todo vaya a ser que los pronunciamientos anteriores solo trataran de salir por la claraboya para no perder votaciones y que ahora se revela la verdadera intención

no parece que el gobierno y el grupo parlamentario que apoya tenga demasiado interés en convocar esta mesa luego analizaremos la enmienda del grupo nacionalista

porque cuando el partido socialista ha tenido responsabilidades de gobierno esto es lo que ha hecho

y por lo tanto podemos decir abiertamente que estamos predicando con el ejemplo es decir que no estamos hablando de cosas que no se hayan hecho en el pasado y que no hayan dado lugar

si eso lo hacíamos en el gobierno y en coherencia en la oposición también pensamos en la importancia que tiene convocar dicha mesa hay en segundo lugar otra razón poderosa creemos y es la situación actual la situación actual yo creo que no requiere

y caminamos hacia una conflictividad cada vez más alta una juridiccialización creciente de las relaciones laborales

continuada la destrucción del empleo eneuskadi es ahora cuatro veces la de españa y en estos momentos se estima que unos cuatrocientos mil trabajadores vascos están

como digo este parlamento se ha pronunciado con anterioridad de modo favorable a esa convocatoria recordar el acuerdo de cinco de mayo por iniciativa de nuestro grupo

recordar el compromiso también del propio consejero el veintiséis de junio preguntas de este parlamentario planteaba que bueno que la mesa no se había podido convocar en el periodo de sesiones como decía el mandato parlamentario pero

se trataría de convocar pero es que además hay otro pronunciamiento todavía posterior y es la diputación permanente el dieciocho de julio

en el tercer punto el parlamento vasco insta al gobierno vasco a mantener la iniciativa en favor de un diálogo social entre las organizaciones sindicales y las patronales para impedir que el fin de la vigencia de los convenios suponga el fin de los derechos de los trabajadores

este acuerdo está suscrito también por el grupo parlamentario nacionalista a dieciocho de julio además de eso hemos formalizado un pacto el partido socialista con el partido nacionalista en el que podemos leer también que ese pacto se hace para impulsar por parte del gobierno vasco

sobre la negociación colectiva en euskadi es decir hay ya toda una serie de compromisos de acuerdos de pronunciamientos que abonan la idea de que es conveniente

el señor consejero en la interpelación dijo que en fin estudiada la situación y vistas

las circunstancias que rodean a todo esto pues que no lo veía apropiado

la convocatoria de dicha mesa y claro detrás de todo esto está y existe y es público y notorio que está

muy concreta que tiene por objeto justamente bloquear y paralizar estos foros estos órganos de encuentro y claro en la medida en que esa estrategia está resultando digamos plausible por mor de que el gobierno no está soslayando ese hecho y diciendo bueno pues los que no quieran venir

pero esto hay que hacerlo no el gobierno ha decidido que bueno que como la atmósfera no es muy adecuada vamos a dejarlo para mejor ocasión y claro mientras tanto la situación es la que es las circunstancias

son malas y lejos de ir mejorando los datos en estos días tenemos noticias francamente abrumadoras

indicadores macroeconómicos pero la realidad prosaica es bastante dura y por lo tanto hay que llevar adelante iniciativas porque esos pronunciamientos de esta cámara

por gusto o simplemente para obligar al gobierno yo creo que hay una convicción de que todo eso sirve para algo quizás no servirá para arreglar todo por supuesto no hay soluciones mágicas en ningún lado

a una serie de cuestiones para ir perfilando y engrasando ya esas relaciones

patronales y para algo tiene sentido el señor ortuzar que hasta hace no mucho se sentaba en esa bancada presidente hoy del partido nacionalista decía el ocho de octubre o sea ayer decía que el acuerdo fiscal alcanzado entre

pues el esquema conseguido es extrapolable al proceso de paz y convivencia y al proceso de autogobierno y decía la receta para cualquier asunto vital de país es la misma

de hecho esa va a ser nuestra medicina diálogo diálogo y diálogo

sería lógico y creo que lo vamos a ser que fuesemos capaces de extender esta nueva cultura de acuerdo en euskadi hombre esta proclama tan bien sonante vale para todo menos para el diálogo social no entonces pongamos en justamente esas convicciones claro el diálogo el diálogo el diálogo que no necesariamente tiene que culminar en un acuerdo porque claro las posiciones de las partes

pueden ser irreconciliables y tal vez no pero la iniciativa del gobierno

digamos decaer tiene que mantener ese pulso es que de lo contrario si no señores del grupo parlamentario nacionalista y señores del gobierno habrá que concluir que esa actitud lo único que hace es reforzar esa estrategia sindical

y la enmienda que plantea esta moción el grupo nacionalista

foros de entendimiento y de encuentro socio laboral supone abandonar compromisos de hasta ayer desdecirse de lo afirmado en fin

nosotros hemos hecho un pacto con ustedes para contribuir a la gobernabilidad para contribuir a la gobernabilidad no lo hemos hecho para darle brillo a la imagen de un gobierno que está inerte no para contribuir a la gobernabilidad y como dice el dicho gobernando que es gerundio eso es lo que hay que hacer miedo a que no se alcancen acuerdos

esto siempre es un desafío y no se sabe realmente donde van a acabar las cosas lo que sí es seguro es que no se alcanza ningún acuerdo si no hay un lugar donde efectivamente se sientan las partes

nosotros pedimos en nuestra moción que esa mesa se convoque en este periodo de sesiones el anterior ya

analizando un poco más diseccionando más en detalle las enmiendas empezaré por la de partido nacionalista

cuando los agentes estén dispuestos a acudir a la misma y existan las condiciones mínimas para que la mesa pueda alcanzar algún tipo de acuerdo hombre esto

escuchadas las manifestaciones de algunos no van a estar dispuestos además claro como no lo explica qué pasa que tienen que estar todos los agentes

los acuerdos más amplios posibles bueno si no son lo totalmente amplios o sea en su totalidad de todos los agentes que intervienen bueno pues que sean

en cambio no aquí lo que parece es que tiene que existir primero disposición de todos los agentes cosa que ya he sabido que no existen todos los agentes segundo condiciones mínimas no sabemos cuáles son

a acudir a esta mesa por lo tanto de su enmienda se destila señora

la impresión tenemos al menos los socialistas porque concuerda un poco con la tesis del gobierno que vista la situación mejor lo dejamos para otro día ahora no nos viene bien claro es que gobernar no suele ser normalmente una tarea fácil claro que no y hay que encarar adversidades contratiempos hay que

muchas aprensiones y muchas reticencias pero eso es gobernar en definitiva

de eh bildu que bueno por otra parte encaja perfectamente en los postulados que ha venido manteniendo siempre lo que plantea la enmienda de bildu básicamente es dar carta de naturaleza a la posibilidad de bloquear

en vía muerta sin ir a ningún lugar por lo tanto nosotros no podemos suscribir para nada la tarea que plantea la enmienda

y además me gustaría también añadir una pequeña anotación porque básicamente podemos estar de acuerdo en el segundo punto cuando dice que el objetivo de la mesa es impulsar un nuevo modelo

inventar cosas tampoco verdad pero mejorar las condiciones

el beneficio de la mayoría del país un nuevo modelo para construir

claro aquí se habla de los derechos de los trabajadores que nosotros por supuesto defendemos a capa y espada pero

la competitividad y la productividad de las empresas también son cosas de las que hay que hablar no solo de los derechos de los trabajadores que para nosotros son sagrados pero obviamente no es la única cuestión

sobre nuestras empresas y sobre nuestro tejido hablar de los derechos de los trabajadores lo vamos a seguir haciendo tantas veces como sea necesario pero es que en ese diálogo social también están esas cuestiones que obviamente la patronal exhibirá

y por lo tanto entendemos que la enmienda de bildu pues bueno entra un poco dentro de ese encaje digamos un poco ya

que plantean la posibilidad de bloqueo la posibilidad de que esto solo sea para defender unos intereses concretos que nosotros compartimos pero claro el diálogo social es para todos por esa razón no podemos suscribir nada de lo que plantea la enmienda del grupo nacionalista porque esto es claramente abandonar

y por supuesto no teníamos posibilidades de transaccionar con el grupo eh bildu porque bueno en este punto las tesis

por esta razón yo les pido a ustedes que apoyen la idea que presentamos la de convocar la mesa de diálogo social

pero creemos que es un modo de mostrar al país por una parte qué opinan unos y otros y que se sepa con luz y taquígrafos qué es lo que piensan los sindicatos qué es lo que piensa la patronal qué es lo que piensa el gobierno y para que a partir de ahí

sea más factible hemos comprometido para los próximos tres años nada menos que seis mil doscientos millónes para la reactivación del empleo y los destinatarios van a ser trabajadores y empresarios

que ir hablando con ellos para efectivamente puesto que son destinatarios de esos fondos que se van a emplear para esa reactivación e ir conociendo de primera mano cuáles son

sobre el destino de esos recursos por todas esas razones creemos señorías que esa mesa de diálogo se tiene que convocar

en legitimación de políticas contrarias a los trabajadores y a las trabajadoras es por ello que no compartimos el análisis y la posición que se defiende en la proposición no de ley

no la compartimos en mayo y tampoco la compartimos ahora no necesitamos ninguna mesa para apuntalar el actual modelo económico y social jaurlaritzak

o dos cuestiones que a nuestro entender son fundamentales y que se deben de tener en cuenta a la hora de impulsar cualquier marco de diálogo social

y esto creo que el gobierno vasco lo debería de tener muy en cuenta es muy importante fijar cuál es el objetivo para nosotros y para nosotras impulsar un nuevo modelo socio económico que vaya en beneficio de la mayoría un nuevo modelo que cree empleo digno y de calidad

público que tome medidas contra la pobreza a través de la defensa de un modelo propio de relaciones laborales y de protección social

a todas aquellas medidas que se vienen imponiendo en detrimento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras

ámbito participe en el caso de los sindicatos si como ha sucedido en la fase anterior no participan aquellos que tienen la representación mayoritaria

y se deberían buscar otras fórmulas de participación porque no compartimos el criterio del partido socialista en ese marco también

las mayorías y las minorías si la mayoría de la parte sindical social en este caso no comparte el funcionamiento y los objetivos de esa mesa es una mesa que nacerá muerta

eztabaidatu genuen momentua guztiz aproposa zen baita de hecho la intervención del proponente señor itxaso destinó gran parte del tiempo a hablar del fin de la ultraactividad de los convenios colectivos haciendo por ello especial hincapié en la necesidad de convocar la mesa de diálogo social para entre todos sus participantes tratar de hacer frente a las nefastas consecuencias de la reforma laboral

que insisto dejaba sin efecto la ultra actividad de los convenios colectivos euzko abertzaleak taldearentzat elkarrizketa behar beharrezkoa da

compartimos la necesidad de llegar a acuerdos creemos imprescindible llegar a consensos

a todos los problemas derivados de la crisis económica y de la falta de empleo y la mesa de diálogo social es uno de los foros específicos en los que se puede tratar la problemática laboral porque a la misma son invitadas patronal

administración y agentes sociales y económicos pero en este momento existe un clima de desconfianza total entre patronal y sindicatos además varios sindicatos mayoritarios en euskadi han manifestado su intención de no acudir a la misma como tampoco lo hicieron en la legislatura anterior

que sí participó en la mesa de diálogo social manifestó que a día de hoy no tiene sentido convocarla

y hoy reiteramos no compartimos la postura de bildu el acudir a la mesa es voluntario por lo que evidentemente quien no quiera ir

no está legitimado para boicotear las convocatorias de la mesa siempre que haya voluntad de acudir debatir e intentar avanzar no creemos en la política de vetos

en general por lo tanto qué vamos a conseguir convocando la mesa

no nos cansaremos por todos los medios legales a nuestro alcance de intentar llegar a acuerdos para evitar las nefastas consecuencias que la crisis económica y las últimas reformas laborales suponen reiteramos la necesidad de diálogo de todos sindicatos empresarios y los diferentes agentes sociales y económicos todos

es necesario volver a crear un clima de confianza mínima

no entendemos la postura de alguna de las partes involucradas que actúan desde la crítica pero sin aportar nada constructivo no están de acuerdo con las consecuencias de la reforma laboral pero no participan en los órganos que tenemos en euskadi para tratar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras vascas están

y según las últimas noticias lab está pensando seriamente

y negarse a hacerlo en los órganos homónimos de euskadi la sociedad juzgará esta manera de actuar la sociedad quiere acuerdos entendimiento no

hay sindicatos muy representativos que no han participado en la mesa de diálogo social y otros que dicen que lo primero es solucionar la problemática de los convenios colectivos por lo tanto con estas posiciones de salida qué sentido tiene convocar la mesa de diálogo social

señor itxaso que se convoque compartirá con este grupo que lo importante es avanzar tener abiertos los canales de comunicación entre los distintos agentes crear el marco de confianza que nos permita llegar a acuerdos y mejorar la situación actual se haga en el marco de la mesa de diálogo social

por eso porque compartimos la importancia de tener abiertos canales de comunicación entre trabajadores patronal administración y agentes sociales y económicos se llamen mesa de diálogo social o de cualquier otra forma estamos de acuerdo

máxime cuando es una petición aprobada por la mayoría de esta cámara pero creemos imprescindible que previamente existan los condicionantes que permitan llegar a algún tipo de acuerdo

cuando existan las condiciones previas será posible convocar la mesa de diálogo social para su verdadera función llegar a acuerdos en el ámbito socio laboral con todas las partes nuestra postura nada tiene que ver con lo que defiende bildu acudir o no a la mesa es voluntario pero no creemos que quien decida pueda pedir que la mesa no se convoque pensamos que la mesa ha de ser convocada para conseguir avanzar en sus objetivos y para ello es imprescindible intentar crear retomar unos mínimos de confianza entre patronal y sindicatos y no duden que el consejero aburto no cejará en su empeño hasta conseguirlo

voy a ser algo más breve que el señor itxaso únicamente diré que votaremos a favor de su iniciativa gracias eskerrik asko

gracias señora presidenta egun on guztioi berriro bien estamos

todos y en muchas ocasiones en un momento de crisis en un momento en el que la coyuntura económica aunque está viendo el final de la recesión en el conjunto de españa en euskadi estamos tardando más en ver ese final y esa tardanza como decía

por ello resulta imprescindible redoblar los esfuerzos en la negociación de las relaciones laborales es necesario más que nunca el diálogo y estamos de acuerdo como decía con lo puesto de manifiesto el señor itxaso en la interpelación y con lo que ha reiterado hoy aquí

en situación peor en lo que al empleo se refiere que en el resto de españa

tendré ocasión de profundizar no mañana porque no puede ser pero sí en próximas fechas de que el empleo en este momento en euskadi y en palabras del propio señor

de algún otro consejero todavía no hemos tocado fondo y efectivamente es preocupante septiembre fue un mes en el que perdimos empleo perdimos más que el resto de españa pero es que además veníamos de un mes de agosto que a diferencia del resto de españa donde se había creado empleo aquí

invertir esa tendencia abandonar esta senda y debemos volver a crecer y volver a crear empleo y para ello es necesario poner en marcha todos los instrumentos precisos y uno de esos instrumentos puede y debe ser la negociación colectiva que la patronal y los sindicatos alcancen acuerdos y ese un marco donde pueda darse esa negociación donde se pueden alcanzar esos acuerdos es la mesa de diálogo como se ha dicho aquí este tema no es nuevo este tema se ha debatido en otras ocasiones cuando en mayo en la comisión

apoyó esta iniciativa y hoy la va a volver a apoyar aquí ya lo dije en ese momento y lo quiero reiterar siempre consideramos que es importante el diálogo social porque ha permitido permite

si siempre es importante como digo ahora lo es más que nunca en un momento de crisis y dificultades económicas

son lógicas en la defensa por parte de cada uno de sus intereses respectivos

es momento de trabajar entre todos de aunar esfuerzos de bandear esta difícil situación económica y paliar las consecuencias de la misma y en ese trabajar entre todos por parte del gobierno vasco

poner aquí de manifiesto que es conveniente volver a convocar la mesa de diálogo social

entre la convocatoria de la mesa y la creación de empleo y podemos estar de acuerdo con ello podemos estar de acuerdo que no es la panacea de la reducción de los problemas es que estaría bueno que lo fuera y que se cometiese la irresponsabilidad por parte de algunos de no convocarla

pero sin ser la panacea sí consideramos que es importante impulsar políticas de diálogo y de concertación yo

que hay otros canales que hay otros foros de confrontación de proyectos de ideas de iniciativas

pero creemos que la mesa puede ser otro foro y que en ese sentido y como digo como hay que redoblar esfuerzos y hay que intentarlo de todas las maneras posibles

usted ha puesto aquí de manifiesto lo que dijo el gobierno que no es conveniente convocarla cuando el sesenta por ciento de la representación sindical pudiera no estar en la sesión pero es que eso no es un problema del gobierno

a nuestro juicio el gobierno vasco debe convocarla independientemente de quien vaya porque como usted bien ha dicho también señora arregi la asistencia es libre y quedará a criterio de los participantes

pero lo que no se puede pretender lo que es inadmisible es que con esa

no se puede aceptar esa intención de boicotear las reuniones que algunos agentes sindicales parecen tener

de una de las partes la posibilidad de celebrar o no la reunión ir o no ir es decisión de los participantes convocarla decisión del gobierno vasco

debe hacerlo aunque algunos amenacen con no asistir aunque algunos quieran determinarla

de algunas centrales sindicales y se está siguiendo su estrategia estrategia que hoy se ha puesto de manifiesto aquí reiterando lo que se dijo en la comisión de mayo

bildu propuso una enmienda en la que precisamente lo que pedía es lo que vuelve a pedir hoy aquí que no se reúna esa mesa

que la mesa no se convocase es decir se deja en manos de una de las partes

las condiciones necesarias y a algunos grupos ya les dijimos

impedir que el resto avanzase y que se pudiera llegar a acuerdos que mejorase los derechos de los trabajadores vascos

y en eso podemos estar de acuerdo con ellos pero lo que no es de recibo es que se pida que no haya posiciones maximalistas a una de las partes pero que la otras sí las tenga

o no se deben dar para que se convoque la mesa de diálogo

a su juicio no se dan no solo no asisten a la reunión que como digo es libre y pueden hacer lo que quieran sino que además vetan

nosotros podemos compartir que la convocatoria de la mesa no puede quedar reducida a una foto a una imagen como también se dijo así que lo importante no es ni la foto ni la imagen sino conseguir un clima de acuerdos y de entendimientos pero también estimamos que el miedo a una imagen

no debe ser impedimento para la convocatoria de la mesa porque el fracaso no se dará en la medida en que las partes acudan o no acudan el fracaso se dará en que si se consiguen adoptar acuerdos o no se consiguen adoptar acuerdos todas las partes a nuestro juicio deben actuar con responsabilidad poniendo lo mejor de ellos para que se den las condiciones adecuadas para que ese diálogo social de frutos que aporten su esfuerzo para que con renuncias mutuas se pueda avanzar y conseguir
trabajar entre todos por el bien común que no es otro que volver a recuperar la senda del empleo nada más muchas gracias eskerrik asko llanos

efectivamente no es la solución a todos los problemas señora arrondo claro cómo va a serlo no hay nada en esta vida que sea

y hay más instrumentos naturalmente que sí pero nosotros en este punto abogamos por uno de los instrumentos

tiene que llevar a cabo estamos hablando de este instrumento en concreto que ya tiene

debatir con ustedes algunas de las cosas que han dicho que no están de acuerdo con el modelo vigente en esto de la mesa bien si nosotros no planteamos cuál tiene que ser el modelo nosotros ahora no somos ni gobierno ni somos sindicatos

en principio no estaríamos luego el modelo tendrá que ser en todo caso el que quieran

nosotros los socialistas luego hace alusión también como un elemento muy importante prácticamente un argumento inapelable

la mayor fuerza sindical bueno a pesar de que en euskadi tenemos mayor afiliación que en el conjunto de españa

dónde está el setenta y cinco por ciento de los trabajadores que no tienen afiliación sindical qué pasa que ellos no tienen derecho a que realmente los asuntos parados de larga duración los que buscan el primer empleo los que o sea nosotros lo que planteamos no son grandes objetivos si ya lo hemos dicho

de momento algo tan sencillo tan simple y tan importante como la cuestión de la negociación colectiva que como usted sabe

ir engrasando las relaciones patronal sindicatos sindicatos patronal para ir viendo cómo se logra que en el tejido

en las relaciones laborales los convenios sectoriales los convenios territoriales sean una fuente de derechos que den seguridad jurídica a los trabajadores y que planteen unas relaciones laborales como es debido claro esos trabajadores que no tienen afiliación también están a merced de todas las contingencias de las que estamos hablando y por lo tanto el hecho de que un sindicato por muy importante que sea y eso me da pie a otra cuestión

tengo yo muy claro si sería honesta pero claro son primera y tercera fuerza sindical si resulta que los que se oponen a estar presentes en esa mesa son la segunda y la cuarta fuerza se convocaría la mesa

yo creo que sí la cuestión es que en este momento debajo de todo este paraguas retórico en el fondo lo que se está es brindando una victoria a esa estrategia de

sí tiene que seguir porque de momento se está dando pie a pensar que efectivamente esa estrategia logra

que aquí no haya interlocución y la interlocución es requisito indispensable para eventualmente lograr acuerdos si es que los hay que eso no está

pero es que si no hay diálogo difícilmente habrá acuerdos

señora arregi hay un clima de desconfianza entre la patronal y los sindicatos bueno esto no es un hecho nuevo esto

de la sociedad industrial tiene que ver con el hecho

es decir claro que hay desconfianza los intereses son contrapuestos es que estamos hablando precisamente de un instrumento para intentar armonizar intereses que son contrapuestos eso es lo que pasa en las sociedades modernas

son contrarios y hay que armonizarlos y hay que buscar los puntos de convergencia y pensar como sociedad pensar como sociedad nosotros lo que estamos diciendo es que en estos momentos el gobierno tiene que mostrar que realmente

pero es que para un gobierno tener iniciativa y mantener el impulso

una tarea que forma parte de la acción de gobierno y desdeñarla diciendo bueno es que no es el momento o no nos viene bien pues claro es verdad

y permítame decirle antes de que se me acabe el tiempo otra cosa señora arregi la pantalla de mi ordenador ahora está apagada

poner el dedo encima y se enciende y aparece el secretario general de ugt raúl arza el cuatro de septiembre o sea también ayer

vamos a dejarlo en que es erróneo porque es verdad que uno no puede leer toda la prensa pero

no es del todo correcta quiero dar las gracias al señor maneiro y a la señora llanos y a su grupo
por el apoyo que nos van a brindar a esta moción que esperamos que salga adelante nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna

la patronal en esta cámara y en este debate no ha tenido ningún solo calificativo

deben de tener todas las bondades del mundo no merecen parece que la patronal ni veta ni bloquea ni impone ni practica nos parece llamativo y bastante vergonzoso

a todo esto confebask no ha tenido ningún calificativo en este debate pero ello sí

por ejemplo que no piensan renunciar a aplicar las medidas que la reforma laboral les otorga qué diálogo social

habrá que hacer un trabajo para obligar a esa parte a que renuncie a esas frases

como la que acabo de decir dicen no pensamos renunciar aplicar las medidas de la reforma laboral

si en vez de ser la mayoría sindical la que dijese que no ve en este momento posibilidades de realizar un diálogo social

que avance que rompa con las reformas sería

qué decir qué haría si confebask y la mayoría de la patronal se negase

no estarían hablando hoy de diálogo social no sé si usted eskerrik asko

legebiltzarburu andrea yo creo que todos los grupos estamos de acuerdo en la importancia que tiene el diálogo social el

económicos sociales patronal trabajadores sindicatos

creo que no hay la menor duda y que el gobierno está trabajando y el gobierno ha mantenido reuniones cuando yo hablaba de la situación de desconfianza entre patronal y trabajadores y en mi primera intervención he hecho referencia a la fecha en la cual tratamos la pnl que en comisión solicitando

dos meses escasos para que finalizara la ultraactividad de los convenios colectivos que era uno de los temas importantes y sobre los que versó la mayoría de incluso de lo que usted manifestó en esa comisión habiendo transcurrido esa fecha

que los sindicatos están trasmitiendo al gobierno en esas reuniones bilaterales que le digo que son constantes con

que lo primero que su primera necesidad es crear esa confianza e intentar desarrollar primero la negociación colectiva para poder acudir a la mesa de diálogo social que necesitan primero trabajar en ello y eso por eso es por lo que el señor consejero le contestó de la forma

las explicaciones que hemos dado nosotros aquí también como grupo parlamentario estamos totalmente de acuerdo en que es necesario hablar y que para intentar llegar a acuerdos evidentemente lo primero que hay que hacer es sentarse y dialogar totalmente de acuerdo con el señor itxaso

la señora arrondo pero también quiero dejar muy claro que no estamos a favor y estamos totalmente en contra de que si una parte

pueda boicotear la llamada la convocatoria de esa mesa pero si los propios sindicatos están diciéndolo y no como

a hablar están diciendo que no es el momento que no lo ven porque no se va a conseguir ningún objetivo pues vamos a seguir dando pasos

es solucionar o intentar por lo menos poner nuestro granito de arena para intentar solucionar la problemática importante que se da en el empleo el gobierno está involucrado y

precisamente que el propio lehendakari intentó antes de que finalizara

sentarse y le dieron portazo pues es que con quien no quiere hablar la verdad que es difícil hablar pero también

en sentido literal a ningún sitio al que no quiera acudir

comparto con la señora llanos es de quien no va no de quien hace la convocatoria y no

para intentar avanzar pero creo sinceramente que hace falta todavía establecer esos mimbres que generen

de verdad con la intención de aunque sea por unos mínimos intentar alcanzar esos mínimos y para ello en este momento los propios sindicatos están diciendo que

que no tiene ningún sentido convocar la mesa por eso creemos que hay que esperar intentar seguir tejiendo esos mimbres de forma bilateral pero siempre negándonos

esté intentando boicotear el acudir a la mesa de diálogo social eta

desde el escaño con su permiso señora presidenta yo estoy de acuerdo con usted

lo ideal es que se den esas condiciones para que en la mesa de diálogo social se llegue a un acuerdo lo que pasa que se puede hacer de cualquiera de las formas se puede intentar

antes y después reunir la mesa social o sea convocar la mesa de diálogo perdón o hacerlo al revés es decir intentar convocar la mesa de diálogo precisamente para llegar a esos mínimos y como usted decía porque de esa manera

de quien no acuda el poderle achacar que no está poniendo por lo menos todo de su parte para intentar salir de la situación en la que está y aquí se preguntaba que nos referíamos a una de las partes sí señora arrondo usted se ha contestado con su enmienda sola usted

diciendo también que si la patronal no quiere ir también que no se convoque no lo décimos nosotros lo dice usted en su enmienda cualquiera de las partes sí sí se la voy a leer por lo menos es lo que pone en la traducción

promotoras para ser efectivas si la mayoría de cualquiera de los representantes considera que no existe las condiciones y garantías suficientes

usted misma se está contestando para usted si la patronal no quiere ir tampoco se convocaría para nosotros se debe de convocar

gracias señora presidenta señorías el pasado día cuatro el grupo popular presentamos una interpelación a la señora consejera señora tapia

en la que preguntábamos si era voluntad del gobierno elaborar una ley de seguridad alimentaria isiltasuna mesedez

ya que no aparecía en el calendario legislativo presentado por el gobierno y tampoco se hacía referencia alguna en el programa de gobierno para la legislatura el grupo popular ya presentó en el dos mil ocho la necesidad de elaborar un proyecto de ley de seguridad alimentaría que fue rechazado por la cámara votamos a favor en el dos mil diez a la enmienda en la que se instaba al gobierno a presentar en la cámara el proyecto de ley de salud pública y seguridad alimentaria

la señora consejera tampoco contestó de manera firme a nuestra interpelación de elaborar una ley de seguridad alimentaria es por lo que presentamos esta moción donde volvemos a insistir en que el gobierno remita a la cámara un proyecto de ley de seguridad alimentaria

la verdad que el interés de los demás grupos en esta cámara

proyecto de ley está resultando extraño porque señorías en mayo de dos mil ocho como les decía el grupo popular presentó una iniciativa una proposición no de ley

y fue rechazada argumentando el grupo nacionalista que la legislación europea era suficiente

interés porque era final de legislatura y no les interesaba

no de ley presentada por el grupo nacionalistas vascos en la que textualmente se instaba al gobierno socialista a que remitiese a la cámara en el plazo de un año un proyecto de ley de seguridad alimentaria y se aprobó

y se aprobó que el gobierno remitiese a esta cámara en el plazo de un año

porque son dos ámbitos que están muy interrelacionados todosnos pusimos de acuerdo en este término

el grupo nacionalistas vascos argumentando que era un momento único para que todo lo concerniente a la seguridad alimentaria quede regulado en una ley y además decía una ley que tuviera los siguientes objetivos

de las administraciones públicas y de los agentes privados involucrados

en la producción transformación y distribución de alimentos que identifique las situaciones de emergencia y sobre todo fije procedimientos generales de actuación

que establezca un régimen de inspección y control para garantizar la calidad y seguridad alimentaria y un régimen de infracciones y sanciones

así como un organismo autónomo que evalúe gestione y comunique los riesgos relacionados con los alimentos y colabore y coordine a las administraciones públicas vascas así como otras agencias y autoridades pero decía más el grupo nacionalistas vascos en este debate

noviembre del dos mil diez decía que cuando en el dos mil ocho rechazaron la proposición no de ley

con una enmienda de transacción remitiendo la seguridad alimentaria

el grupo nacionalista decía en el dos mil diez que aunque el gobierno no tuvo en consideración

y no aprobó que se elabore una ley el gobierno no se quedó ahí el gobierno nacionalista dos mil ocho en aras de lograr una mayor seguridad alimentaria y con la intención de aprobar una ley

del año dos mil nueve copia de la iniciativa del partido popular claro y a través de ikt

jurídico para que elaborara el anteproyecto de ley un borrador y que supuestamente lo dejaron en la mesa del gobierno entrante gobierno socialista y concluía

la idea la voluntad y la necesidad de una ley sí que la tenía y la veía el gobierno anterior y sí que lo vemos ahora impresionante documento señorías qué decía que el grupo socialista en el año dos mil diez

y que con eso se daba mayor impulso a la seguridad alimentaria

en esta materia qué tenemos hoy

elaborado por el anterior gobierno nacionalista que supuestamente

y que el gobierno nacionalista se ha encontrado un borrador de proyecto de ley de salud pública y seguridad alimentaria elaborado por el gobierno socialista

y tenemos una consejera que no sabe no contesta señorías parece un esperpento

en la interpelación que el interés del partido o del grupo nacionalista en la seguridad alimentaria o en legislar sobre seguridad alimentaria es intermitente y creo que me quedé corta porque esto parece una mala fiesta señorías qué poco respeto qué poca vergüenza

unos servicios privados para elaborar un proyecto de ley para luego colgarlo en mi programa electoral qué poca vergüenza luego venir a decir que la seguridad alimentaria como ya lo hacen las diputaciones y el gobierno vasco pone el lazo está todo controlado señorías

el grupo socialista y se ha unido bildu que hay que decir que a aralar

también votaron a favor en el dos mil diez para que se traiga a esta cámara una ley de salud pública y seguridad alimentaria se lo recuerdo han presentado una moción y qué dice en la moción pues vuelven a remitir la seguridad alimentaria

y un plan de seguridad alimentaria y yo me pregunto cómo van a regular ustedes las sanciones

con un plan qué pasa que

que el lunes la señora consejera va a contratar unos servicios jurídicos ajenos a la casa para elaborar otro borrador de proyecto de ley señorías

se califica por sí solo y cuando yo el otro día decía

la señora consejera me decía que no haga demagogia sin tener criterio

se llama demagogia a esto cómo lo llamamos eskerrik asko

presidenta buenos días la ley estatal siete barra dos mil once de cinco julio de seguridad alimentaria

indica que en el marco de convivencia de los ordenamientos jurídicos se ha tenido muy presente la existencia del ordenamiento jurídico comunitario y el principio de primacía del mismo respecto a los ordenamientos nacionales por tanto lo que la ley está poniendo en valor

de la seguridad alimentaria tanto a nivel autonómico como en las relaciones con la unión europea

con el asunto de la seguridad alimentaria y con la propuesta del partido popular de elaborar una ley en el plazo de un año y hay que decir en primer lugar que el tema de hacer o no una ley sobre seguridad alimentaria no ha sido un asunto

legislaturas anteriores a estas en las que los grupos proponían la presentación de una ley sobre seguridad alimentaria dependiendo del partido que gobernaba en el momento

y si el gobierno no era nacionalista como ocurrió en la anterior legislatura ante el gobierno socialista fue el partido nacionalista vasco quien presenta esa iniciativa sobre una ley

en lo que al fondo del asunto se refiere los socialistas en las dos ocasiones en las que hemos tratado este tema tanto el veintitrés de mayo del dos mil ocho

alimentaria donde se recogiera el control de la seguridad alimentaria

que los socialistas propusimos incorporar a la ley de salud pública la seguridad alimentaria

es poner en valor la necesidad de abordar este tema con un planteamiento global e integral que comprenda toda la cadena desde la producción primaria

con objetividad y sin crear falsas alarmas mire hace un año se celebro una sobre la producción de alimentos y seguridad alimentaria en la que participó el sector agro ganadero y alimentario del país vasco la administración pública las empresas agentes sectoriales en aquellas jornadas concluyeron que la seguridad alimentaria

integral que englobe conceptos como bienestar y salud animal alimentación animal salud vegetal producción de alimentos nutrición humana medio ambiente

intentaban que se promoviese la cultura de responsabilidad colectiva los socialistas compartimos aquellas conclusiones de esa jornada

alimentaria en ella confluyen múltiples actores en una interrelación compleja operadores económicos consumidores y administraciones públicas

en una interrelación tan grande que debe promoverse una cultura de la corresponsabilidad

más allá de la parcela de actividad de cada uno de esos operadores porque las consecuencias sanitarias las consecuencias económicas y las consecuencias sociales de estos problemas que se originan a través de la inseguridad alimentaria no se circunscribe únicamente a su ámbito de influencia

un trabajo coordinado de todas las administraciones competentes en el ámbito de la seguridad alimentaria

hacer partícipes a los operadores involucrados a lo largo de toda la cadena alimentaria con el fin de aunar esfuerzos y aunar sobre todo garantizar la seguridad alimentaria

un cambio importante en la producción de alimentos y también un coste económico que no podemos desdeñar porque ese coste económico se ha añadido a las empresas del sector alimentario

los recursos que se disponían por parte de las administraciones públicas

riesgos alimenticios es mucho más reducida hoy y en ese sector de la alimentación que en cualquier otro aspecto del consumo

y de consumo de alimentos están generando nuevos riesgos cuya evaluación y correcta gestión es una parte sustancial razonable de salud pública y de producción agraria la calidad y la seguridad alimentaria como elementos ineludiblemente unidos deben ser por lo tanto elementos de primordial preocupación y una prioridad para todas las instituciones públicas

donde las administraciones competentes compartan un enfoque global e integral de la seguridad de la cadena alimentaria

de una estrategia de sinergia y complementariedad además tiene que contar

de la ciudadanía hoy el interés público es mucho más sensible a temas como la seguridad la calidad y la diversidad de la producción agro alimentaria

de alimentos permiten que el interés público se centre también en aspectos medio ambientales en aspectos éticos de la producción agro alimentaria

la salud o incluso el bienestar de los animales por eso ahora lo importante no es si el partido nacionalista vasco o el partido popular están en el donde dije digo digo diego

que en seguridad alimentaria se ha llevado en el país vasco y evaluando los instrumentos y estrategias de intervención hagamos posible el mantenimiento y la mejora continua de esa intervención administrativa de esa intervención institucional y que lo hagamos posible además cuanto antes es decir

y no luego para lamentar incidentes yo creo que un plan integral que desarrolle

es un plan que va a tener flexibilidad que va a estar menos encorsetado que una ley señora lópez de ocariz mucho menos encorsetado y un plan que pueda ser revisado

cualquier ley o cualquier artículo de una ley y yo creo que se está trabajando satisfactoriamente en materia de seguridad alimentaria por parte de los agentes de los operadores y las administraciones y que la opción más adecuada no deja de ser ese plan ese consenso al que hemos llegado entre los grupos de esta cámara un plan interinstitucional completo

en el que se cree el criterio de tolerancia cero y el máximo celo

yo creo que con este plan si realmente somos capaces de superar esos litigios de antaño de quién es más que quién o quién presentó antes que quién una iniciativa si logramos separarnos de ese prurito demagógico y realmente ir a lo práctico

habremos dado un gran paso muchísimas gracias eskerrik asko corcuera

gure gizarteak ez zuen elikagai arazo larri izan independientemente de lo variables que podamos ser

y que aquel departamento de agricultura gestionó extraordinariamente bien la crisis tanto

al hilo de aquella crisis el departamento de agricultura impulsó un órgano con exclusiva dedicación a la seguridad alimentaria

elika fue tomando forma constituyendo comités técnicos y de expertos en las diferentes facetas a abordar hasta llegar a su actual composición y modelo de gestión por cierto alabado allende nuestras fronteras las coordinaciones intra e interinstitucionales a pesar de que inicialmente no eran las mejores

nola ez el grupo socialista la enmendó solicitó un plan de seguridad y el grupo nacionalista junto a ea y ezker batua

fantástico terminó con una transacción entre el grupo socialista y el tripartito que solicitó remitida al parlamento un plan estratégico de la industria y se hizo

pasado bastante más de un año del comienzo y tras observar con cierta preocupación que las relaciones intra e interinstitucionales y sobre todo estas últimas

desde el grupo nacionalista se solicitó la presentación de una ley de seguridad alimentaria

claramente los campos de intervención de las diferentes administraciones subrayando qué era lo que más nos preocupaba se trataba de amachamartillar por ley lo que no parecía funcionar a través de elika seguramente no hubiera sido suficiente pero era un toque de atención la transacción definitiva entre el grupo que yo represento los socialistas y eusko alkartasuna quedó en solicitar una ley

y seguridad alimentaria que el grupo popular apoyo como ve en definitiva pedir una ley en exclusiva de seguridad alimentaria nunca se ha hecho en este parlamento

la historia continua con su interpelación y consecuente moción que este mes ha presentado y en la que sin más ambages

un proyecto de seguridad alimentaria monda y lironda ha rebajado sus pretensiones del año dos mil ocho

terminada la historia creo llegar a la hora de alguna reflexión creo que aunque usted se hará la no convencida le he explicado la razón de fondo por la que nuestro grupo solicitó la elaboración de la ley en la pasada legislatura

aunque a nadie se le escapa que a esa razón de fondo se le pueden unir razones de oportunidad legítimas y propias

no eran las principales no obstante si usted tanto empeño tiene en la ley tan segura está de que la alimentación estará definitivamente asegurada con la ley por qué no aportó lo suyo la pasada legislatura al gobierno vasco cuando usted era la socia de privilegio del mismo

lo que no le quita que contenga legitimidad ni interés no obstante insisto en que no es imprescindible tener una ley para hacer las cosas bien con normas

e instrumentos jurídicos y administrativos es posible hacerlo con el mismo sino superior rigor y con una mayor flexibilidad no le digo que siempre así sea

bere horretan lege oso garatu behar izateko hori alde batetik por otro lado la comisión europea aprobó el seis de mayo de este año o sea antesdeayer un paquete de medidas encaminado a fortalecer la aplicación de normas de salud y seguridad para toda la cadena alimentaria

que le recuerdo se compone de setenta disposiciones para convertirlas en solo cinco esta propuesta está en fase de examen por el resto de instituciones de la unión europea

a esa tramitación y recoger las modificaciones que seguro se van a producir lo que hemos hecho ha sido proponer al gobierno aspectos de mucha mayor practicidad

así como solicitar al gobierno que aborde la regulación de producciones alimentarías de venta en proximidad adaptando a nuestra legislación las propuestas comunitarias que permiten

se comercializan en circuitos cortos y con determinadas proximidades al lugar de producción hemos visto cómo en europa en países con sociedades consumidoras exigentes facilitan la comercialización y transformación de ese tipo de productos generando economías locales y rurales enriquecedoras y diversificadoras

lo que no entendemos es la necesidad de una ley de matar las moscas a cañonazos cuando no parece que al menos hoy en día resulta imprescindible ni aporte nada nuevo a una normativa y un modo de hacer suficientemente garantista eskerrik asko

ha dejado el trabajo realizado por el gobierno del señor

a cero ni una sola mención a un borrador importante un documento válido se había pasado a consulta a distintos organismos de la comunidad autónoma vasca

no ha existido esa etapa no ha existido el gobierno del señor lópez para usted

así no necesita usted enemigos un plan no puede establecer

por ejemplo no puede establecer unas sanciones para quien incumple y eso es una parte fundamental en todo este proceso

yo no he puesto ninguna duda

pero tendrán que reconocer que esos trabajos los hace principalmente las diputaciones forales y que lo que hace el gobierno vasco es ponerle el lazo en elika y quiero recordar en el dos mil siete

creo que era un treinta de octubre uno de noviembre por ahí

resolver la situación rápidamente elika tardó quince días en poner

menos mal que este tema lo llevan las diputaciones porque saben hacer porque tienen una trayectoria y porque tienen unos profesionales

pero el gobierno vasco en todo esto solo hace recoger la información

lo que hace cada uno aquí y señor tellería ha omitido usted una parte muy importante en esa justificación

para que el gobierno haga un proyecto de ley ha dicho que ante la falta de criterio del gobierno socialista que no que en el diario de sesiones

dicen ustedes que en el dos mil ocho acto seguido después de haber aprobado aquí ustedes su enmienda de transacción remitiéndonos seguridad alimentaria

el departamento a través de ikt unos servicios privados para que elabore un borrador de proyecto de ley de seguridad alimentaria que luego lo incorporan al programa electoral pero que lo dice aquí

es interés que no ve interés oiga ustedes qué mentían en el programa electoral a los ciudadanos qué era una farsa su programa electoral

por favor pero que tiene un papel usted pues lo entiendo

como la copa de un pino imposible de entender en un partido que siempre ha tenido una trayectoria bastante coherente en el gobierno otra cosa es que la compartamos o no

responde a lo que está pasando un año en blanco desorientados y resolviendo aquí de mala manera situaciones para no he perdido sí he perdido he ganado punto

que el partido popular no vamos haciendo carreras por las sedes de los partidos para ver quién presenta más iniciativas quién gana más iniciativas

haciendo escaletas de quién presenta más iniciativas

coherencia y objetivos claros a eso le llaman ustedes demagogia eskerrik asko

sí gracias presidenta señora lópez de ocariz vaya berrinche que lleva usted porque prácticamente me manda usted a conflictos casi en mi partido pero bueno vamos a

de ese gobierno socialista que lideró una euskadi moderna

así que ahí tiene las actas y puede usted comprobarlo en cada una de mis intervenciones y como no iba a ser menos en esta legislatura también alabo lo bueno que hizo ese gobierno que fue mucho señora lópez de ocariz mucho a pesar de también el partido popular el objetivo de toda política sobre seguridad alimentaria

y los intereses de los consumidores al tiempo que garantizar un buen funcionamiento del mercado interior y a mí no me cabe duda de que se ha trabajado seriamente en el campo de la seguridad alimentaria en euskadi la pasada legislatura el estado actual de la seguridad alimentaria en el país vasco tiene un nivel satisfactorio

alimentaria han descendido de forma significativa en los últimos años ahí están los datos pero también es verdad que hay que seguir haciendo esfuerzos que el gobierno vasco

de la agenda científica como la del programa económico de este gobierno vasco y la mayor sensibilidad que hoy tienen los agentes y los operadores de la cadena alimentaria

por un celo extremo en la responsabilidad que tienen las administraciones públicas el gobierno vasco las diputaciones los ayuntamientos respecto a toda la ciudadanía y respecto al asunto de la seguridad alimentaria porque mantener un alto nivel de seguridad alimentaria corresponde no solo a las administraciones públicas sino también

y se lo dedico señora lópez de ocariz por eso insertar la seguridad alimentaria en la ley de salud pública desde una visión parcial sin una óptica integral

no nos parecía lo más oportuno ni tampoco el encorsetamiento en una ley

y resulta además esa normativa de obligado cumplimiento por lo que tampoco se iba a promover

una ley mejoras sustanciales en el procedimiento que se debe llevar a cabo con el asunto de la seguridad alimentaria dedicado a usted y así ya me evito lo del tema de los conflictos

estudiar y aportar propuestas a ese plan integral de seguridad alimentaria que nos permita abordar con rigurosidad este asunto y finalizo mostrando mi satisfacción por haber llegado a un consenso mayoritario en esta cámara

un consenso que además coincide plenamente con la propuesta socialista que realizábamos en el año dos mil nueve en nuestro programa electoral que era señora lópez de ocariz realizar un plan de seguridad y calidad

que revisara con carácter permanente los sistemas de control de la seguridad y calidad de los alimentos coordinando las actuaciones de las diferentes administraciones y el sector privado y una que es muy disciplinada asumía aquel programa electoral

eskerrik asko mahai burua anderea me voy a intentar dar prisa porque se oye de hablar de alimentación con estos ruidos que se

pero estoy dolido está usted enfadada y

estamos haciendo cada uno lo que creemos que debemos hacer sí le voy a decir una cosa

no es cierto porque la lengua azul la

puede venir con lo que quiera no voy a recordar la historia pero aquí no ha sido

pero bueno y luego

y dice que es para ensalzar el trabajo maravilloso que hacen todos los demás menos el gobierno para eso se hacen monumentos la ley no es para ensalzar a nadie la ley es para regular las cosas que funcionen

se ha leído la ley de política agraria alimentaria más de la mitad de un régimen sancionador en alimentación está en esa ley mire

no es la ley un elemento imprescindible para regular una materia y hacerlo con seriedad se puede hacer

lo que hemos pactado una gran mayoría de este parlamento de hecho

una en cataluña que dedica dos terceras partes a regular

científicos que ya los tenemos aquí regulados por decreto y otra tercera parte a generar una agencia que aquí ya la tenemos creada en formato de fundación

entrevera la salud labora la salud ambiental la vigilancia epidemiológica y al final la seguridad alimentaria regula tantas cosas que no creo que es eficiente

tan meticulosa en las demandas de desarrollo de la ley de política agraria

se haya olvidado de desarrollar el artículo cincuenta y seis no quiero ser mal pensado pero podría entrever una aviesa intención

una ley completa como esta cuando una ley previa pedía el desarrollo de uno de los aspectos que más nos llevan preocupando durante años que es la regulación y reglamentación de los productos en pequeñas explotaciones y en circuitos cortos

es así vuelvo a insistirle si tanto interés tiene y ha tenido y probablemente lo seguirá teniendo

elaborar esta ley por qué no aprovecho la oportunidad de la pasada legislatura en cualquier caso como usted lo que ha ido buscando es que yo pase vergüenza y que

ya le he dicho que no la hay ahora si en caso de que insiste que he visto que sí

pues voy a intentar apelar al exterior a gente más sabia que yo y le voy a dar tres frases darcourt dijo mejor es contradecirse que petrificarse

dijo la contradicción es la raíz de todo movimiento y de toda manifestación vital luego lo cogió marx y lo convirtió en que la contradicción es la síntesis

dijo en la declaración de los derechos del hombre se olvidaron de incluir el derecho a la contradicción

tengo más no le voy a aburrir mi conciencia está tranquila espero